errealitate gordin eta prekarioaz ari naiz a veces las cifras valen más que mil palabras cuarenta y uno coma dos por ciento esa es la cifra de paro juvenil en euskal herria estamos hablando de jóvenes

dieciséis y veinticuatro años un dato que nos provoca una mezcla de preocupación y vergüenza

nos provocan las medidas que los gestores del sistema proponen para la juventud precariedad temporalidad contratos basura o minijobs etts

la esclavitud de los contratos en prácticas recortes en las prestaciones sociales o el secuestro de la educación pública mediante subidas criminales de tasas y saqueo de becas

el cincuenta y ocho coma ocho por ciento de la juventud restante

con lo que solo el dieciocho coma tres por ciento de los y las jóvenes menores de treinta años

a la banca usurera o pagando un alquiler que duplica o incluso triplica la media de los alquileres europeos más de veintidós mil jóvenes de entre dieciocho y treinta y cuatro años en euskal herria obligadas a exiliarse laboralmente a otros países lo que supone un doce coma dos por ciento más que en el ejercicio dos mil once aunque es necesario aquí realizar una aclaración en otros países europeos puede que haya más trabajo depende de donde vayas pero la precariedad es la misma el problema no es solo el índice de paro sino las condiciones laborales con las que tiene que lidiar esta generación único objetivo beneficio empresarial a costa de nuestra esclavitud

en palabras de nuestro apreciado compañero sabino cuadra esto parece la mili servicio precario obligatorio hasta los treinta y cinco años

sacar pecho hablando de emprendimiento juvenil y fomentando el individualismo y la idea de que ser clase trabajadora es un merecido castigo por aquellos que no tienen fuerza de voluntad gazteak

la condición de ser joven y mujer encontrándonos en una situación todavía más cruel en tanto en cuanto todos estos índices se ensañan aun más con nosotras

por el sistema patriarcal al que estamos sometidas que distan mucho de esa supuesta igualdad al que se nos quiere vender desde los partidos políticos que hasta ahora han copado las instituciones así las mujeres sufrimos en mayor medida los recortes como los relativos a la ley de dependencia mayores tasas de desempleo y peores condiciones laborales careciendo entre otras de reconocimiento alguno ni legal

que son la base de la sostenibilidad de la vida e incluso afrontando próximamente una regresión legal en nuestro derecho elemental a decidir sobre nuestros propios cuerpos con la reforma de ley del partido popular qué tiempos son estos que vivimos en los que tenemos que defender

y una vez más venimos a este atril a defender lo obvio la necesidad y la urgencia

de las y los jóvenes vascos necesidades de un sector de población que sufre con especial

porque pretendemos que esta ponencia sea el foro de la juventud una ponencia que defienda la participación activa y de calidad de la juventud vasca en la toma de decisiones políticas que nos atañe para que seamos las propias jóvenes las que dibujemos

que nos garantice vidas dignas de ser vividas eajrekin erdibidekoa adostu

y de la futura ley vasca de juventud porque no podemos olvidar que han habido dos propuestas de ley que han fracasado por algo que a nuestro juicio es elemental la participación

así como la vinculación de sus propuestas a las políticas públicas en definitiva por no haber planteado una ley desde la juventud para la juventud

las y los jóvenes y escuchemos de primera mano aquello que tienen que decirnos

es mucho tengan una cosa clara las jóvenes tenemos cabeza tenemos cerebro no somos idealistas y utópicas aunque no está mal serlo

y que desde luego ese tránsito pasa por generar alternativas propias al modelo que nos imponen

de eso no les quepa la menor duda la clase política tiene mucho miedo al empoderamiento de la juventud y por eso desarrolla políticas que bloquean nuestro empoderamiento ya que son conscientes de que ninguna de las políticas que están llevando a cabo serían aceptadas por nosotras y nosotros porque tenemos alternativas verdaderas reales y efectivas para erradicar la precarización de nuestras vidas

tan irresponsable es quien plantea políticas antijuveniles como quien impide que nosotras que la juventud podamos decidir de manera directa sobre nuestro futuro

un nuevo modelo basado en la justicia social un modelo en el que la participación de la juventud

y en este sentido necesitamos con carácter urgente la soberanía plena de euskal herria para poder plantear libremente las políticas que verdaderamente incorporen la perspectiva de género y juventud a todas las áreas de actuación un modelo totalmente opuesto al que nos pretende imponer el régimen franquista español

procesa y criminaliza a la juventud vasca llevándola a un tribunal de excepción a madrid

por el simple hecho de haberse atrevido a ejercer militancia política y el derecho a la rebeldía

es una contradicción casi biológica y en este momento lo obvio y lo revolucionario es que puede acudir a este parlamento la juventud vasca

no quiero finalizar mi intervención hecha desde la impotencia que siento como mujer joven y además inmigrante en un país

las exigencias a las instituciones públicas para que transiten hacia una vida que merezca la pena ser vivida para que ello será fundamental que nosotras mismas decidamos

cómo trabajar y cuánto ganar que podamos emanciparnos teniendo un entorno sostenible medioambientalmente para ello que tengamos garantizadas una educación o una sanidad públicas y de máxima que garantice la normalización lingüística y la cultura como motores de transformación social que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos y que se blinden nuestros derechos civiles y políticos gazte bezala aspertuta gaude klase politikoaz

muchas gracias señora presidenta voy a ser muy breve porque comprenderán ustedes que después de la soflama que hemos escuchado aquí pues ya se acabó el debate

yo creo que es inaceptable tener que soportar aquí

que hablan de esclavitud yo no sé para quién habla usted no sé para quién hablan ustedes señores de bildu

la sociedad vasca es una sociedad de imbéciles que los jóvenes vascos son idiotas usted se cree que puede bajar a esta tribuna a hablar de esclavitud de secuestro de la educación

usted de dónde ha venido aquí para hablar de esta manera en esta cámara de dónde ha venido hablar de exilio laboral cuando se refieren a los jóvenes hablar de nuestra democracia

es un régimen franquista hoy pero

cuál es la venezuela de chávez la cuba de castro corea del norte cuál es su alternativa usted que dice que pinta este panorama negro que dice

viene aquí en la cámara de la tierra que a usted le ha acogido a decir todas estas burradas de esta sociedad

las cosas que usted ha dicho desde esta tribuna y desde luego después de todas las cosas que usted ha dicho

tal y como ha planteado este debate lo que me sorprende es que el partido nacionalista vasco

pero bueno aquí asistimos a este acuerdo entre el pnv y bildu que después de escucharla a usted desde luego yo entiendo muchísimo menos

con el grupo socialista para que efectivamente de una manera razonable y sensata se pueda hablar de los problemas que tienen y que afronta la juventud vasca a través de una ley plantear al gobierno que en el plazo de seis meses pueda traer una ley de juventud para que podamos discutir aquí sin demagogia

señorías si repasamos la política de juventud en el país vasco

la trayectoria de los jóvenes se podía calificar como previsible y por qué la defino así

directa con contratos estables que permitían diseñar una carrera profesional y como consecuencia de todo ello era factible el acceso a una vivienda y optar por la formación de una familia

de los últimos años como son la situación de desempleo empleo precario o la baja remuneración han dado lugar a lo que se reconoce como la sociedad de la incertidumbre o del riesgo se ha producido un retraso considerable en la edad de mancipación familiar

hoy día podemos hablar de una nueva situación de la juventud caracterizada por una mayor complejidad de la vida profesional un retraso en la emancipación familiar y en definitiva

juvenil hoy en día podemos detectar en la juventud una grave situación de dependencia

el desajuste entre la edad en que los jóvenes desearían emanciparse y la edad en

de verdad pero esta grave situación de dependencia no solo es debido a la posibilidad o no de la emancipación si

nos lo estamos engañando hay muchas circunstancias personales familiares culturales económicas o incluso sociales

en la sociedad me refiero por ejemplo a la pertenencia a núcleos familiares desestructurados o carentes de medios económicos que garanticen la formación

me refiero al acceso cada vez más temprano a la adolescencia motivada por diversas razones cambios en el sistema educativo académicos

sobre aspectos relacionados con la sexualidad con las drogas entre otros en consecuencia ante la precaria situación que vivimos los jóvenes y las dificultades a que nos enfrentamos

que cambiemos la perspectiva desde donde se están trabajando las políticas de juventud porque pensar que a través de la oferta del ocio y de servicios se iba a poder solucionar nuestra situación es un síntoma de no conocer la realidad

de juventud que permitan afrontar los problemas que afectan a las personas jóvenes

vayan adaptándose a las nuevas situaciones porque solo partiendo de un concepto de política integral de juventud se podrá superar el enfoque exclusivamente culturalista y centrado en el sistema del tiempo libre

encaminadas a promocionar iniciativas de igualdad y emancipación como aquellos ámbitos en que inciden directamente en la promoción de la condición de la juventud por todo ello

trajo a esta cámara la ley vasca de juventud por todo ello los socialistas continuamos creyendo que la ley vasca de juventud

para impulsar la política integral de la juventud que abarca por un lado las medidas para posibilitar la autonomía la emancipación y la integración de la juventud en la sociedad mediante la planificación ejecución y evaluación de las políticas transversales de juventud y por otro la promoción juvenil a través de actividades servicios y equipamientos para jóvenes todo ello llevado acabo mediante procesos y con cauces

y siempre con el fin de proteger y facilitar el ejercicio de los derechos y libertades como ciudadanos que son

primero facilitar la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes mediante la consolidación de las políticas transversales y coordinando

segundo garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de servicios y equipamientos destinados específicamente a la promoción juvenil

ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca mediante la creación de canales estables también en el ámbito local dando cabida igualmente a la juventud

así un objetivo claro y explícito de la política de juventud ha de ser eliminar los obstáculos que dificultan o incluso impiden

puedan salir del hogar de origen para constituir su propio núcleo familiar dicha ley debe dotar a la juventud de aquellas herramientas que le ayuden en su desarrollo como persona joven

promoviendo su autonomía personal y económica que le llevará a su emancipación y deberá hacerlo huyendo de planteamientos excesivamente proteccionistas que puedan retrasar

en la sociedad en este sentido creemos que la administración general de la comunidad autónoma del país vasco precisa de mecanismos de gestión que garanticen el efectivo desarrollo de sus competencias y que agilicen los distintos cometidos que se le encomienda

cuya finalidad es facilitar con estabilidad y continuidad que las niñas los niños los adolescentes los jóvenes se desarrollen y disfruten de su infancia adolescencia y juventud en su doble dimensión por un lado como etapa vital con valor significado en sí misma en la que cada persona

sujeto de derechos de ciudadanía y parte indispensable del tejido social por otro lado

y vínculos sociales hace posible un proceso progresivo de emancipación es decir una transición exitosa y satisfactoria a la condición adulta

y su puesta en práctica en un proceso personal de vida y cómo no continuamos creyendo que la ley debe contemplar la creación del instituto vasco de la juventud organismo autónomo adscrito al departamento competente en materia de juventud que dotado de la autonomía

se propone y aporta una adecuada coordinación asegurando y reforzando la transversalidad de las medidas a la población joven un instituto vasco de la juventud que tenga como objeto planificar programar coordinar ejecutar y evaluar la política integral de la juventud y las medidas

así como las medidas de promoción juvenil la señora urrea en la justificación de su proposición no de ley dice que el gobierno vasco ha manifestado una y otra vez

es una prioridad para su gobierno y compartimos con ustedes

porque detectar no detectamos ningún planteamiento concreto ante la

por eso señorías el partido socialista y el partido popular hemos presentado

instar al gobierno a plantear la elaboración de la ley vasca de juventud por último señora urrea sí me gustaría comentarle en relación a su primera intervención en política

usted acaba de pedirnos a todos los partidos en este parlamento que dejemos fuera de la politización a la juventud y qué es lo que ha hecho usted con su intervención hablar de juicios franquistas de detenciones etcétera mire

por lo tanto no critiquen nada al resto de los partidos cuando son ustedes los primeros una cosa es ser revolucionario y otra cosa es defender a personas que forman parte de una banda armada

se hace defendiendo siempre los valores democráticos muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

arrakasta izango badute nuestra enmienda tenía dos puntos un primer punto en el que instábamos al gobierno vasco

como hemos manifestado en más de una ocasión entendemos que es un instrumento necesario y valioso como lo han sido los anteriores planes que

desde el empleo la educación la salud el consumo el ocio la vivienda

y el gobierno está trabajando en ello y además dentro de unos días comparecerá en comisión para dar cuenta de ello en lo que respecta al segundo punto por un lado mostrábamos

diputaciones ayuntamientos y el propio gobierno vasco y por otro lado definíamos el objetivo que a nuestro entender debía de tener esa colaboración y era dotar de coherencia a las políticas de juventud gainontzeko zuzenketei

lege proiektuari le quiero recordar que esa votación del proyecto de ley traído por el gobierno lópez fue el principio del fin de un pacto pp pse baino

afortunadamente esta sociedad la sociedad vasca es plural y además es inteligente no hay más que ver diez escaños veintiuno escaños

si alguien en esta cámara tiene la potestad para hablar de la juventud esa será precisamente la más joven de esta cámara

a una parte de la juventud en mis intervenciones represento a mi grupo porque consideramos que es la juventud quien tiene que venir a representarse a sí misma y por ello hemos planteado la ponencia lo que pasa es que es normal

a que la ciudadanía diga lo que piensa porque tienen muchas vergüenzas que esconder tienen miedo a que planteen alternativas que desde luego

el modelo que algunas personas plantean simplemente quiero decir que hay que superar determinadas barreras hay que ir más allá basta de hablar de necesidades de la juventud vamos a traerlas vamos a ver qué nos van a decir

cambio absoluto traer a las personas a las instituciones hasta ahora no se ha hecho esto claro es normal efectivamente ha tenido que venir euskal herria bildu a plantear cómo no acercar a la juventud para que sean ellas quien de manera

no ustedes desde su papel adulto realizando reformas que absolutamente acaban con nuestro futuro que acaban

y señores son ustedes los campeones del mundo de destrucción y precarización del empleo y desde luego

de ver su modelo hegemónico que desde luego a nivel personal

zurea da hitza sí pues muchas gracias señora presidenta es que por no darle más importancia a este asunto que no lo

usted desaprovecha una oportunidad muy valiosa para hablar de los problemas

y la manera de afrontar el futuro en las políticas de juventud creo que es una manera bastante tonta de desaprovechar el tiempo y las iniciativas

muchas gracias señora presidenta señora barriozabal la verdad que usted tiene un papel hoy que no me gustaría estar en su pellejo para nada

y por eso dar usted lecciones al partido socialista ninguna ninguna y le digo por qué es verdad que en marzo este partido presentó una proposición no de ley instando al gobierno para que elaborara la ley de juventud es cierto pero si no ha venido a esta cámara ha sido porque el partido socialista a seguido trabajando en otros diferentes temas que también son muy importantes para los ciudadanos vascos

el quitar el día de euskadi eso es lo que importa a los ciudadanos vascos por lo tanto lecciones las mínimas dice que

yo en mi intervención he utilizado partes de la exposición de motivos de la ley vasca de juventud que presento el lehendakari lópez

porque me lo creo me creo que la juventud y me creo en el trabajo que ha hecho este gobierno socialista me creo el trabajo que ha hecho el lehenedakari lópez que hizo la consejera urgell

y como me lo creo vengo aquí a defenderlo por lo tanto

que baje dios y que lo vea como lo he dicho otras veces no quieren la ley de juventud no solo eso agarran a cualquier cosa a una ponencia que les plantea eh bildu por lo que a lo mejor podría darse el número que esta cámara aprobara

a dicho en su intervención que están de acuerdo y que creen que es necesario una ley el partido socialista no está en contra de la creación de esta ponencia y por eso nuestro voto

somos de las únicas comunidades autónomas que no tenemos una ley vasca de juventud

y dilate esto más aún quien lo van a pagar son los jóvenes van a pagar los jóvenes vascos

a traer las personas al parlamento infórmese bien la anterior

se realizó a través de un proceso participativo donde participaron desde agentes

hasta las diputaciones infórmese infórmese no solo eso sino que el pnv no quiere tampoco

no solo eso fíjese lo que le importa la juventud al partido nacionalista vasco que la dirección de juventud la ha fusionado con

qué pasa no tiene tanta importancia la juventud en este país y que no me digan que es la reestructuración y por ahorrar porque quitan de un lado pero crean por otro lado otros organismos

ustedes del partido nacionalistas se creen que dar una subvención al egk es suficiente

que ustedes tanto defienden la presidenta en esta cámara dijo de la necesidad de la aprobación de una ley vasca de juventud por lo tanto

que esta enmienda a la totalidad que el partido socialista ha presentado es la misma que hemos presentado otras veces pero vuelvo a decir porque es lo que creemos no como la enmienda de totalidad que presentan ustedes que es una enmienda vacía de contenido qué es dotar de coherencia las políticas de juventud que me va a decir que del gobierno el año que llevan bueno menos de un año en el gobierno no son coherentes en sus políticas

qué pasa qué durante este tiempo no han escuchado ni los han respetado por lo tanto sean ustedes coherentes que dan un poquito de pena lo que ustedes presentan con estas actitudes los jóvenes lo que van a llegar es cómo van a creer en la política o en este gobierno

por lo tanto nosotros defendemos y seguiremos defendiendo que en esta comunidad autónoma es necesario una ley vasca de juventud y señora

la juventud no lo da la edad la edad es un número que pone en el dni yo me parece que el discurso que usted
no es de una persona tan joven como lo que es usted muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

nos da la sensación que hay determinados grupos con cierta amnesia urrea andrea zu eta euskal herria bildu

aritu zara ustedes pretendían crear un instituto y para ello estaban dispuestos

de los principios que ustedes mismo se habían dado previamente para la elaboración de los presupuestos

saltándose todas las normas que ustedes mismos se habían dado con la no creación de nuevos organismos autónomos por tanto usted me dirá

por favor cierta coherencia es lo que pedimos al partido socialista ordutik hona zuek lege proiektua